sí gracias presidenta esta ley que se pretende no es una ley

mejor dicho no es una ley solo contra las mujeres es una ley o pretende ser una ley contra la sociedad contra la sociedad y laica no solamente por lo tanto como aquí se ha dicho un ataque a las mujeres cuando se ataca a las mujeres o a sus derechos se ataca de la sociedad es una ley por lo tanto que es un ataque a la sociedad plural y laica evidentemente es también un ataque específico contra las mujeres porque pretende tratarlas como menores de edad menores de edad que supuestamente no entienden lo que hacen

por expertos o por profesionales o por el propio gobierno

un ataque contra las mujeres pero no solo un ataque contra las mujeres sino contra el conjunto de la sociedad y a día de hoy hay una mayoría social amplísima muy contraria a este anteproyecto que se ha planteado lo triste señora llanos es que españa en fin no evolucione

en este caso se produce una involución evidente en lugar de mantenernos

o si acaso ir hacia una ley con mayor seguridad jurídica y que respete y proteja mejor los derechos individuales va en sentido contrario el resto de los países van justo hacia leyes más

más abiertas poco a poco en algún caso pero van

y ustedes plantean justo lo contrario plantean retrotraernos a la españa

esta es la realidad el anteproyecto es incluso más restrictivo que el que se sigue en muchos países de latinoamérica nos empareja con bolivia

con polonia vamos hacía atrás ustedes proponen que vayamos hacia atrás y además de proponer que vayamos hacia atrás nos dicen que no podemos debatir sobre la cuestión

que no queremos debatir resulta que traemos el asunto a este parlamento pero usted en lugar de defender el anteproyecto que es lo que supuestamente le tocaría en lugar de defender ese anteproyecto que por otro lado es indefendible lo que viene a decirnos es que tengamos paciencia a que el ejecutivo lleve este asunto al congreso es que no queremos que este anteproyecto llegue al congreso

este es el asunto que nos quieren dejar en ridículo países europeos y del mundo más modernos y más avanzados señores del partido popular voten por favor a favor de esta propuesta

tanto crítico que había ahí dónde están los críticos del partido popular dónde están los críticos

a este insulto a la inteligencia debatan levanten la mano por favor y voten a favor

que hemos alcanzado no pretendemos privar al ejecutivo de su capacidad de iniciativa señora llanos lo que pretendemos es que no siga adelante con esta iniciativa en concreto que ya la ha defendido aquí y allá el señor gallardón él ya la ha defendido nosotros lo traemos aquí a este parlamento para decir que no estamos de acuerdo

y usted dice que se propone volver al consenso pero si este anteproyecto no lo defienden ni siquiera las bases del partido popular pero si no lo defiende nadie pero si rompe el consenso pero si en lugar de proponer una propuesta que vaya a mejor van a peor pero si militantes y votantes del partido popular se tiran de los pelos al ver lo que ustedes han propuesto este es el asunto

las leyes evidentemente pueden cambiarse pero ya digo para perfeccionar la protección de las libertades individuales y para mejorar la seguridad jurídica de nada me vale que se nos diga que el partido popular es coherente o consecuente o que este asunto lo llevaba en el programa electoral cosa que por otro lado es falso

no se especificaba qué era lo que se proponía pero aunque lo llevara y qué que lo lleve en el programa electoral no estamos de acuerdo con lo que se ha presentado por eso defendemos esta transaccional

propuesta pero que es una propuesta que la hemos defendido siempre y en todo lugar también en el congreso de los diputados y yo mismo en esta cámara ley de plazos que deje a la mujer gestante la decisión definitiva sobre la interrupción del embarazo dentro de un plazo legal mayor que el plazo actual de catorce

concretar hasta dónde nos vamos pero esto lo he defendido yo aquí mismo y en otros momentos sin tutela del gobierno ni de expertos

esto es lo que nosotros pretendíamos la ley actual es

cabe y lo que toca hoy aquí sobre todo y por encima de todo es decirle al gobierno del pp que guarde este disparate en un cajón

y que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que comparten esta postura nuestra a la que hemos alcanzado por otro lado un acuerdo con el resto de grupos en todo caso

la reforma de la legislación del aborto de gallardón supone una vuelta a la doble moral y al entorno legal indefino que marcó el desarrollo

eso es evidente los cambios propuestos en la misma vulnera los derechos de las mujeres a su autonomía a la salud a la intimidad

a estar libre de discriminación y a estar libre de un trato inhumano cruel y degradante

estableció un entorno legal nítido respondiendo a una sociedad española que se ha mostrado reiteradamente a favor de una regulación clara

de los derechos a las mujeres supone además un marco legal con grandes dosis de discrecionalidad y de oscuridad normativa

fue en la misma línea que el resto de los países siguiendo un camino que ya se inició en europa en mil novecientos noventa y cuatro porque la situación ha cambiado en lo referente a la regulación

y se inició un camino diferente desde mil novecientos noventa y cuatro no es verdad que la ley del dos mil diez no se ajuste a lo que marca el tribunal constitucional en lo referente a la protección de concebido y no nacido porque

en esa sentencia del tribunal constitucional se establecía que había que proteger el derecho y daba prioridad y primacía a los derechos constitucionales de la mujer a su derecha

de la personalidad entre otros ustedes dicen que estaba en su programa pero como muy bien ha dicho el señor maneiro estaba recogido de una forma muy genérica ustedes podían haber optado entre una ley muchísimo menos restrictiva una mera corrección pero no han optado por la ley por una anteproyecto el más restrictivo posible por otro lado la contrarreforma de gallardón

supone su completa derogación lo que supone también eliminar el derecho a la información a la educación sexual y a la planificación familiar en definitiva

sino que también en una ley contra los derechos sexuales y reproductivos de toda la población

el número de abortos no se reduce el número de abortos con esta reforma las españolas que puedan viajar a otros países para realizar el aborto lo harán porque la mujer que quiere abortar lo va a hacer y la mujer que no pueda por carecer de recursos estarán abocadas a

creando un sistema de dos clases donde mujeres sin recursos también se quedarán sin opciones este es el modelo que están creando ustedes de sociedad

no tienes derechos los derechos para el que se los pueda pagar la ley de plazos vigente es la opción

por eso mi grupo parlamentario es la única opción que apoyará nosotros no rechazamos debatir se lo he dicho en mi primera intervención lo que no vamos a entrar es un debate de supuestos es que

y el resto de la sociedad está defendiendo ahora mismo la continuidad de la ley del dos mil diez que está dentro de lo que se llama el sistema de plazos hoy todos los partidos juntos representados en este parlamento vamos a decir que no otra vez a esta ley

hasta la última o a este anteproyecto de ley decimos que no a este anteproyecto

espíritu y pedimos que se retire todos menos lógicamente ustedes el grupo popular y todos nosotros estamos representando a la mayoría de la población vasca dejen de escudarse

y retiren esta reforma porque la misma está rechazada por el ochenta por ciento de la ciudadanía vuelvan al consenso de la ley actual ustedes que es un consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios de la mayoría de la sociedad de la mayoría de los profesionales del sistema

por encima de las leyes de la democracia siguen siendo la misma derecha de siempre con la misma forma de gobernar por imposición y contra la voluntad de los ciudadanos

esta reforma por vergonzosa y radicalmente machista y apoyaremos la enmienda transaccional con el resto de grupos y quiero terminar agradeciendo el esfuerzo a todos los grupos que han realizado

que siga adelante y pedir que se retire este anteproyecto de ley que va contra los derechos de las mujeres y contra el derecho de la sociedad española

que estamos debatiendo sobre un proyecto que todavía no existe pero es una realidad está aquí

del anteproyecto en las cortes de madrid y gracias a los votos del partido popular no ha sido así sigue adelante por lo que no

nos habla nuevamente del programa electoral de su partido

y le he echado una ojeadita y efectivamente la página ciento ocho

es una frase nada más dice cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reformar la protección del derecho a la vida

a sus votantes cómo se iba a cambiar esta ley orgánica de arriba a abajo y de abajo a arriba si es que igual si les llegan explicar en el programa pues un poquito más y mejor cuál era

de personas hace referencia también a la doctrina del tribunal constitucional sobre la defensa de los derechos tanto de la mujer como del concebido

sí que existe existe la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de naciones unidas de mil novecientos noventa y cinco

y se reconoció la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad constituyendo una base fundamental para la consecución y disfrute de otros derechos derechos fundamentales humanos y también existe la resolución dieciséis barra siete del consejo de europa del año dos mil ocho donde se acordó que el aborto es un derecho

se debe garantizar y respetar por los estados miembros

y segura qué le pasa al partido popular que desoye toda esta normativa europea e internacional también habla de lo dispuesto en el artículo quince de la constitución refrendado por el tribunal constitucional

en nuestro ordenamiento jurídico y la vida de las mujeres que se pondrán en riesgo practicando abortos ilegales porque se practicarán

de la constitución el catedrático de filosofía del derecho de la universidad de alicante el señor manuel atienza

que les lea en particular no es posible afirmar que un feto de menos de tres meses

a no ser que se recurra a razones religiosas que por tener ese carácter deben dejarse al margen del discurso público lo que lleva a concluir que

es razón suficiente como para justificar la permisión jurídica del aborto

la permisividad de las conductas abortivas requiere además la presencia de otros factores como el peligro para la salud de la mujer o la existencia de malformaciones en el feto este señor es toda una eminencia y por último también hablaba

de zapatero no es mi labor defender a zapatero pero hombre aunque sea cierto que no lo incluía en su programa electoral ni habría una demanda social aún así

no es el caso esta reforma no tiene ni pies ni cabeza retiren el proyecto de ley orgánica porque esta sociedad se lo va a agradecer

gracias señora presidenta fíjense si algunos ya tienen preconcebido lo que tienen que decir que se traen hasta la réplica escrita da igual lo que digamos los demás dice que no entramos en el debate mire señora arrizabalaga dice que lo llevábamos en el programa electoral con una frase

que los votantes del partido nacionalista vasco muchos no entienden su postura porque lo que hacen es tener muy claro que existen dos bienes jurídicos en conflicto que es de lo que se trata porque de eso se escapa de eso se escapa muy hábilmente

existen o no existen dos bienes jurídicos en conflicto y no me venga con lo de la vida porque le diré

de la señora ministra aído de que era un ser vivo el producto de la concepción pero no un ser humano que no sé

lo que era el comité de bioética dijo claramente que el producto de la concepción era un ser humano que luego se tuviese que sacrificar porque se consideraba superior el derecho de la madre vale pero que era un ser humano lo decía

lo llevamos en la página ciento ocho pero usted cree que los que votaron al partido popular pensaban que si llegábamos al gobierno reformábamos la ley del aborto lo que íbamos a hacer ere una ley de plazos más expansiva que el actual

los que votaron al partido popular porque llevábamos en el programa electoral que íbamos a reformar la ley del aborto sabían cual era nuestra postura la que hemos tenido siempre la de mil novecientos ochenta y cinco la de la conciliación de los dos derechos esa

la postura que tuvimos cuando se modificó en el dos mil diez la ley aído esa la que mantuvimos en el voto particular esa la que está contenida en el tribunal constitucional que por cierto señora sánchez ya se pueden ahorrar el debate en el tribunal constitucional

que la ley del dos mil diez es absolutamente constitucional pues para qué llámenle y díganle oiga

y no se trata de moral señor maneiro se trata de una modificación impuesta ya le digo por la constitución esa constitución que a usted tanto le gusta en ocasiones

lo que establece el artículo quince y las sentencias del tribunal constitucional hasta en tres ocasiones señalando que es necesaria una conciliación de los dos bienes jurídicos y claro que claro que hay que llegar al consenso pero dicen que retiremos pero ni no se ha presentado todavía si no se ha presentado todavía si no ha entrado en el cámara del congreso de los diputados todavía

el trabajo que tiene que hacer el trabajo legislativo que tiene que hacer un anteproyecto que es ser sometido a información y yo lo que sí le pido al gobierno del partido popular es que tenga en cuenta lo que esos informes dicen de lo que lo tuvo en cuenta el gobierno del partido socialista más de lo que lo tuvo en cuenta informe contrario del consejo fiscal no hubo

el consejo de estado puso reparos hasta a el título porque le dijo que no se podía hablar de interrupción del embarazo

y ustedes hicieron caso omiso a todos esos informes les dio igual

y qué hicieron ustedes nada adelante con los faroles hubo pronunciamientos del consejo de médicos

pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres provocaba una gran inseguridad qué hicieron ustedes adelante con los faroles

si lo estamos sometiendo a todos los trámites si estamos diciendo desde el minuto uno que estamos abiertos al consenso a la modificación de las reformas

eso sí que existen dos bienes jurídicos que por supuesto hay que conciliarlos

de verdad hay cosas que a una siendo mujer le ofende y que la izquierda se arrogue como el gran defensor de las mujeres no mire

que se pueden sentir ustedes por el suyo igual que no tienen el patrimonio de nada que el patrimonio de defender a las mujeres la tenemos todos

lo que pasa es que ustedes solo existe defensa y solo existe legitimidad cuando procede de ustedes y a nosotros aunque nos la hayan dado a las urnas no la tenemos

podríamos decir lo mismo nosotros de la ley del dos mil diez que era una contrarreforma

y hablan ustedes de que la mayoría social mire yo la mayoría en esto se vota cuando nos sometemos a las elecciones y luego también a través de encuestas y hasta en el país si uno sumaba

cuántos estaban a favor de la ley de supuestos o en contra de la ley de plazos más de cincuenta por ciento

solo el treinta por ciento estaba a favor de la ley de plazos la que salió publicada el fin de semana pasado y por cierto el cuarenta y seis por ciento de los votantes socialistas ya pueden ir echándolos por retrógrados por ser contrario a los derechos de las mujeres

creo que ustedes lo que tienen es miedo a debatir miedo al debate y no se puede retirar nada porque no ha comenzado y nosotros
se lo digo desde ahora sí queremos que la reforma llegue al congreso que se tengan en cuenta las aportaciones que hagan todos los informes

mucho mejor que la actual nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta

gracias presidenta volvemos a hablar aunque a algunos no les guste la idea de fraude fiscal de lucha contra el fraude fiscal de compromiso contra el fraude fiscal

parlamento en la situación actual para luchar más y mejor contra el fraude fiscal la historia de upyd es breve pero intensa

prácticamente defendiendo algunos asuntos que van incorporándose en el discurso de algunos otros grupos políticos

de impulsar una reforma fiscal en euskadi de la necesidad de impulsar la reforma del sistema tributario vasco de la necesidad de poner en marcha cuanto antes para luchar mejor contra el fraude un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal

también durante años de la necesidad de habilitar algún sistema de interconexión informática de datos tributarios para lograr ese objetivo y también hemos defendido prácticamente en solitario pues que las competencias fiscales que a día de hoy están en manos de las juntas generales de los territorios históricos pasen a ser competencia de este parlamento y otras cuestiones semejantes o relacionadas sobre la cuestión esto está ahí está en la historia

y durante largos años desde diferentes partidos políticos se nos decía insistentemente que no hacía falta reforma tributaria que no hacía falta plan conjunto de lucha contra el fraude

y efectivamente a día de hoy prácticamente todos también nos siguen repitiendo que las competencias fiscales están bien donde están están bien en las juntas generales

por cada uno de esos objetivos también por el último de esos objetivos

pasen a este parlamento obviamente sabiendo la fuerza que tenemos un solo parlamentario de setenta y cinco como suele recordarme el consejero

especialmente siempre que pierde los debates contra un servidor y en la réplica recuerda aquello de cero concejales cero junteros un solo parlamentario

y las propuestas y en este caso un solo parlamentario ha conseguido firmar una transaccional que espero que sea apoyada por el resto de grupos que viene a ser un paso adelante un paso pequeño pero un paso necesario para luchar

ya le digo señora gorospe que si upyd hubiera tenido treinta y ocho parlamentarios no hubiera firmado esa transaccional que hemos firmado con ustedes evidentemente pero ya digo que

un paso un pequeño paso y un recordatorio de lo que este parlamento aprobó que también es importante en aquel pleno monográfico de fiscalidad del día veintiséis de septiembre bueno como decía a partir de ahí a partir de esas propuestas llegó el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi se planteó un debate monográfico y en ese debate monográfico también creo recordar que de las treinta y dos propuestas de resolución

socialista de euskadi upyd no tuvo ningún problema sino todo lo contrario para votar a favor de quince de ellas pidiendo la votación por puntos considerábamos que eran medidas acertadas y no tuvimos ningún problema en votar quince

propuestas de resolución a partir de ese momento esas propuestas de resolución que se acordaron y que se aprobaron en este parlamento digamos que son ya mandato parlamentario y

de ese mandato parlamentario para recordar al gobierno qué es lo que está haciendo

en nuestra opinión no está cumpliendo ese mandato parlamentario en concreto la propuesta de resolución número seis o la está cumpliendo a paso de caracol de manera muy lenta hicimos una interpelación al consejero hace un par de semanas donde le preguntábamos qué ocurre con las medidas que iban a tomarse en relación

y la interconexión informática de las bases de datos tributarias digamos que la respuesta del señor consejero fue básicamente la misma que le había dado al señor pastor mes y medio antes algo así como que seguimos trabajando teniendo en cuenta que durante años no se trabajó es un paso

que el gobierno vasco trabaje en la lucha contra el fraude

parecer es un paso y necesario la realidad es que treinta años después seguimos sin tener un plan conjunto de lucha contra el fraude y seguimos sin tener

informática en tiempo real de las bases de datos tributarias esta es la realidad treinta años después todavía no lo tenemos no sé si al partido socialista esto le parecerá

y que por lo tanto esa propuesta de resolución no se está cumpliendo qué nos decía el señor consejero que efectivamente nos recordaba que ese día veintiséis de septiembre

durante el mes de octubre se crea la comisión de lucha contra el fraude es decir hace falta un mes entero para crear una comisión se nos dice que durante el mes de noviembre las tres diputaciones forales y el gobierno vasco nombran a los miembros de la comisión entero para nombrar a los miembros de la comisión esto es así y se nos insiste que siguen trabajando y estamos ya prácticamente en marzo estamos en febrero y todavía no se ha puesto en marcha hace escasos días hemos tenido conocimiento que las diputaciones forales han debido aprobar un intercambio de datos fiscales bastante limitado

no cumpliría lo que se le pide en esa propuesta de resolución de ahí también que nosotros pedíamos a través de esa moción la comparecencia de los diputados de hacienda de las correspondientes diputaciones para que se nos expliquen en este parlamento cuáles son esos convenios que se han firmado

en definitiva esa es la moción que nosotros habíamos planteado hau da guk eskatzen duguna alde batetik eusko legebiltzarrak fiskalitateari buruzko

honi buruzko azalpen guztiak eman ditzatela esto es lo que le pedíamos al gobierno finalmente hemos llegado a una transaccional con el partido nacionalista vasco que puede significar un pequeño paso una forma de decirle al gobierno que tiene que acelerar los pasos para que este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal se ponga en marcha

comparezca en este parlamento cuanto antes cuando este plan esté ya elaborado para dar todas las explicaciones que se recogía en esa propuesta de resolución y que consideramos que el consejero debe dar por transparencia para saber qué es exactamente lo que se está haciendo

de la iniciativa presionar al gobierno que comprendan que nosotros no miramos para otro lado que estamos vigilantes en relación a lo que este parlamento aprueba seguiremos insistiendo en esta cuestión porque hay muchísimos pasos que dar

a la misma muchísimos pasos que tienen que darse algunas de estas propuestas están recogidas en esas propuestas de resolución otras no pero en todo caso nosotros siempre y cuando la mesa del parlamento nos lo permita seguiremos trayéndolas en forma de proposición no de ley o

muchas gracias señora presidenta señor maneiro no es que algunos no queremos hablar de estos temas es que estamos aburridos de hacerlo

es distinto solo por recordarle en el último año hemos tenido dos debates monográficos con sus propuestas de resolución no sé cuántas mociones y no sé cuántas

le tengo que decir que su fuerza para plantear lo que nos plantea hoy no es que sea usted un parlamentario si usted lo que quiere es cambiar la constitución que es la que da a los territorios históricos la competencia foral

usted lo que tiene que hacer es plantearlo en el congreso de los diputados y plantear la modificación de la constitución allí cosa

me consta que hayan hecho entonces por mucho que salga usted aquí mes tras mes a decir

pues queda muy bien que usted lo diga pero usted no está intentando modificar eso

plantee usted en el congreso de los diputados que las competencias fiscales tienen que estar en este parlamento y que lo vea yo

pidiendo en el congreso de los diputados modificar la constitución española para que las competencias fiscales residan en el parlamento vasco

y lo demás con perdón fuegos de artificio

que sea necesario un plan conjunto de lucha contra el fraude de las tres diputaciones forales no entiendo que sea necesario

que es tan necesario pues parece evidente

agencia tributaria del estado con navarra con canarias incluso con francia cosa que no le he visto plantear a nadie aquí salvo a nosotros que nosotros sí que lo planteamos en su día

tampoco tiene esa necesidad de hacerse un plan conjunto porque las inspecciones fiscales en cada zona en cada territorio evidentemente tienen que incidir y lo hemos dicho más de una vez en función

y habrá zonas muy agrícolas en la que evidentemente la inspección fiscal tendrá que ir dirigida a ese sector

y por lo tanto lo que sí hace falta es que cada hacienda tenga el plan adecuado para intentar atajar el mayor número de fraude fiscal que se pueda y le tengo que decir que en fin que

usted quiere presionar al gobierno le pide al gobierno que comparezca en comisión o le pide las explicaciones que quiera al gobierno o le insta

estamos los parlamentarios y estamos los grupos parlamentarios y respecto a lo que al final vamos a plantear que es lo que ya hemos planteado y lo que ya hemos aprobado y lo que ya está en marcha

con lo que se plantea en la transaccional y que la novedad sea

pues eso está en manos de cualquiera de los setenta y cinco parlamentarios que estamos en este parlamento para pedir que comparezca sobre el tema que cada uno considere más oportuno

creo que es suficiente eskerrik asko damborenea jauna

entorpece la lucha contra el fraude fiscal horrela izango balitz

estoy impresionado por la enmienda transaccional es todo un ejercicio de habilidad para conseguir que la resolución seis del pleno de política de fiscalidad del veintiséis de septiembre

se traduzca en una enmienda transaccional cambiando las palabras es

la resolución número seis pero con las palabras primero las han desordenado y luego las han ordenado en una cosa que se llama enmienda transaccional

todo un gran debate todo un gran avance en esta materia con esta transaccional que nos han planteado en uno de los puntos de la

recordarán que se planteaba que cuando se tienen ya los resultados estos resultados de la lucha contra el fraude fiscal hay que llevarlos a las juntas generales hay que traerlos al parlamento y hay que dar cumplida información bien se dice que fuera el consejero

ahora el que venga yo no habría pensado nunca en otra persona para

también me parece un hallazgo se mira y se encuentra al consejero

bien si este es el avance efectivamente es como para impresionar yo creo que estamos ya en una fase

diferente a esta a la de ratificar los acuerdos a la de repetir los acuerdos a la desordenarlos para volverlos a ordenar con los mismos términos yo creo que estaríamos ya en la fase de ir viendo

y de ir viendo resultados porque efectivamente del veintiséis de septiembre a aquí ya ha pasado un tiempo

que merecen un impulso merecen ser pulidas y entre otras

de datos cuál es ese acuerdo entre las distintas instituciones cuál es su alcance hasta dónde llega para qué sirve y como esto otras herramientas que ya están planteadas en aquel pleno de política fiscal pero además yo creo que sería bueno que

de la política y de los instrumentos de la política de esta cámara del gobierno

fiscal de las diputaciones de las juntas generales

algo más que debates repetidos sobre el fraude fiscal porque yo creo que en política cada vez que hablamos mucho sobre fraude fiscal en realidad lo que estamos poniendo de relieve estamos ante un problema que no terminamos de hincarle el diente estamos ante un problema en el que debatimos y debatimos porque hay una cierta incapacidad para ofrecer resultados para evitar esa lacra

del fraude fiscal y yo creo que deberíamos de ser una vez que tenemos los instrumentos

deberíamos de ser mucho más productivos deberíamos de ser mucho más rentables para la sociedad

repetitivos y estar menos en el juego de las palabras y más en el juego de las acciones todo el mundo sabe a estas alturas que hay un importantísima fraude fiscal todo el mundo sabe que hay oportunidad y herramientas

los socialistas lo sabemos bien no nos vamos a poner tantas medallas como el señor maneiro que es el descubridor de la lucha contra el fraude fiscal y el impulsor de todas las políticas

enhorabuena déjeme que le felicite nosotros sabemos muy bien

significa la lucha contra el fraude fiscal y lo que significa el haber trabajado para poner en marcha las herramientas que hoy están en curso llevábamos tiempo años planteando que

hubiera una comisión de lucha contra el fraude fiscal donde estuvieran las instituciones donde estuvieran los tres territorios y donde estuviera

la interconexión de datos actuaciones conjuntas objetivos conjuntos llevábamos años planteando que hubiera más medios

para la lucha contra el fraude fiscal fíjese con la cabeza me dice que no le voy a decir algo un poco más contundente para cuando usted había nacido ya existía la lucha contra le fraude fiscal me refiero para cuando había nacido a la política porque no se crea que es tan joven para cuando había nacido a la política ya existía la lucha contra el fraude fiscal

y existían planes en las juntas generales existían comisiones discretas además

ya sabemos que todo el mundo tiene la pretensión en algún momento de su vida de descubrir el mundo aunque el mundo estuviera descubierto y esto le pasa un poco

invito a esta cámara invito a todos los grupos a que busquemos un espacio de encuentro discreto donde empecemos ya de una forma

sin pausa a analizar si los objetivos son correctos

si se están alcanzando resultados es decir no creo que hay que poner en la escena de lo público aquellos aspectos sensibles de la lucha contra el fraude fiscal

una cierta materia reservada hasta conocer los resultados creo que no hay que poner en pista

y objetivos que tiene que tener la lucha contra el fraude fiscal y probablemente este es un debate que en mi opinión

a sacarlo de este escenario solamente de retórica para llevarlo ya a un escenario de acción de resultados y esta es la apuesta que desde luego hacemos los socialistas esta es la invitación que hacemos los socialistas ahora si se trata de tener aquí un tiempo pues ya sabe que todos los jueves hay pleno que la iniciativa de cada cual

cada uno se empeñe en abordar pero no para hacer un acto productivo ni un acto nuevo ni un acto con resultados sino bueno para estar aquí un poco

lo que no se encuentra en fin me parece que la enmienda transaccional no aporta nada es innecesaria creo que el marco de trabajo tiene que ser otro y lo hemos apuntado si les parece podríamos trabajar y profundizar en ello que probablemente iremos mucho más al grano

bilduko kide sí señor maneiro la diputada de hacienda de gipuzkoa

diputada que atendió la invitación de este parlamento para explicar el trabajo de su departamento en la lucha contra el fraude no hace falta que le explique los motivos por los que los otros dos diputados no vinieron como usted diría cosas del entramado institucional

efectivamente nuestro compromiso es también seguir trabajando de ahí que

interpelaciones mociones o proposiciones no de ley sobre la cuestión o incluso que presentemos enmiendas cuando hay otros grupos que plantean iniciativas semejantes en lugar de no proponer ningún tipo de enmienda como el partido socialista verlas venir y luego encima

de no hacer lo suficiente cuando se ha evidenciado de manera muy clara que la decisión del partido socialista de no presentar ningún tipo de enmienda su objetivo era no incomodar al partido nacionalista vasco para no romper su pacto en relación a la fiscalidad

con esa habilidad que le caracteriza viene aquí a decirnos que lo hemos presentado o lo que hemos pactado con el partido nacionalista vasco era insuficiente

había dos alternativas que saliera su enmienda su voto o que no saliera nada esa era básicamente las alternativas que había o que saliera la enmienda del partido nacionalista vasco o que no saliera nada y ustedes iban a votar a favor de la enmienda del partido nacionalista vasco nosotros hemos conseguido cierto avance cierto compromiso al partido nacionalista vasco en todo caso vamos a ver el señor damborenea se aburre con estos temas no ve ningún problema ni en la fiscalidad ni en la lucha contra el fraude lleva diciéndolo no sé si se lleva aburriendo desde el año dos mil nueve o mucho antes si por él fuera estaríamos en fin en los años ochenta todavía haciendo las enmiendas con máquina de escribir

nada en la lucha contra el fraude siempre dice que no hay que hacer absolutamente nada pero es curioso porque a la vez dice que el único grupo que ha presentado durante estos cinco años una iniciativa para defender un plan conjunto de la mano de la agencia tributaria y de la mano de navarra es

pero a continuación lo curioso es que usted considera que ese plan conjunto no es necesario

ha sido el único grupo que ha presentado esa propuesta en el pasado y no solo eso sino que además firma la transaccional con nosotros donde proponemos efectivamente eso y no solo eso sino que ustedes que nunca quieren mover un dedo para hacer nada

a pesar de que dos semanas antes habían dicho aquello de que era un pacto entre políticos para no hacer nada pero en fin allá cada cual con su coherencia tenemos otro problema a parte del ritmo

de algunos partidos políticos tenemos el problema de que el partido nacionalista vasco no cree que el fraude fiscal sea un problema en euskadi y posiblemente lo vaya a decir en la réplica la señora gorospe tenemos el problema de que el partido nacionalista vasco pretende entorpecer la lucha contra el fraude fiscal lo lleva haciendo años tenemos el problema de que el pnv

un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal en esto coincide con el señor damborenea y tenemos el problema finalmente que el partido nacionalista vasco considera que no es necesario

este es el problema que tenemos y por lo tanto nuestra misión es intentar arrastrar al gobierno y al partido nacionalista vasco a hacer algo o algunas cosas que

y muchas cosas más efectivamente muchas cosas más que se pueden hacer

del parlamento vasco nos las bloquea esta es la realidad iniciativas concretas para luchar contra el fraude fiscal que no tiene nada que ver con la puesta en marcha de un plan conjunto

muchísimas cosas más y otro problema que tenemos es que hay una mayoría parlamentaria que no quiere mover un dedo para modificar el entramado institucional

en aquel pleno monográfico y en muchas otras ocasiones medidas contundentes para reformar ese entramado ningún otro grupo político apoyó ni una sola de esas medidas pero en fin debe ser que para ustedes es más razonable

de dos millónes de habitantes tengamos cuatro parlamentos tres gobiernos que cada diputación haga su plan contra el fraude que luego haya que crear una comisión

los miembros de esa comisión tienen que ser nombrados por cada una de las diputaciones que luego hay que hacer un plan conjunto que tenga en cuenta los planes parciales en fin que

como consecuencia del entramado institucional que tengamos el órgano de coordinación tributaria que tengamos el consejo vasco de finanzas todo esto para ustedes es razonable para nosotros evidentemente

cambiarlo evidentemente la transaccional podía haber sido mucho mejor podía haber sido más ambiciosa pero desgraciadamente no hemos contado con la ayuda del señor txarli prieto que no sé si se aburre no lo ha dicho pero parece que sí

no hacemos todo lo posible cuando realmente es una pose porque usted lo que no quería era incomodar al partido nacionalista vasco por eso no ha propuesto

para poder sacar adelante nuestra moción esa moción o incluso otra

con el partido nacionalista vasco en fin la conclusión es que el partido socialista de euskadi

se conforman con ir al ritmo de caracol que no solo camina lentamente por cierto tiene otra serie de características por todos conocidas y ustedes

o la interconexión informática de bases de datos tributarias
en tiempo real maneiro jauna amaitzen joan mesedez todo esto en fin parece que ustedes lo han abandonado
seguiremos insistiendo para intentar arrastrarles a unas posiciones que consideramos que son imprescindibles para modernizar euskadi y luchar mejor

que si el plan conjunto era tan importante nosotros lo hicimos como enmienda la primera vez que se planteó este tema y dijimos oiga porque las tres diputaciones si es tan importante pues con más administraciones tributarias no si es tan importante yo creo que nos quedamos solos

y yo le voy a decir una cosa es decir yo no sé usted exactamente qué conoce del fraude fiscal y cómo se lucha contra el fraude fiscal no sé qué conoce yo le tengo que decir que en fin que nosotros siempre hemos confiado en los

que están en esa tarea y en las diputaciones forales gobierne quien gobierne yo no tengo ninguna duda de que la inspección fiscal de gipuzkoa funciona correctamente

aunque gobierne hoy quien gobierne pero tampoco tengo duda de que la mayoría de los inspectores hombre siempre puede haber ovejas negras

también entre los inspectores pero bueno pero que básicamente funciona lo mejor que saben

ni cuáles son los medios que tiene que utilizar igual funcionamos de otra forma y pensamos que son los inspectores fiscales los que tienen que decir qué medios necesitan yo no he oído nunca que tuvieran problemas de interconexión

le voy a decir algo yo lo que conozco por ejemplo es más vizcaínos que pueden tener bienes en cantabria de los que puedan tener en gipuzkoa o en álava a efectos de que un plan conjunto de álava bizkaia y gipuzkoa pueda aportar algo y conozco más guipuzcoanos que tienen bienes

o en francia que los que puedan tener en álava o en gipuzkoa digo a efectos de combatir el fraude fiscal se lo pongo como ejemplo

es que se lleva desde hace un tiempo haciendo mucha demagogia en este parlamento básicamente con este tema y nosotros lo que sí sabemos es que la lucha contra el fraude fiscal no es mejor porque se hable mucho de ella o se diga lo que hay que hacer o como alguien pidió en su momento que los planes de inspección de publiquen en los boletines oficiales

digo yo porque es que aquí algunos confunden la publicidad y la información como una gran medida

a lo mejor lo que hay que plantearse porque sí es novedoso la noticia esa de inspectores fiscales diciendo

ya que se lo plantean ellos habría que planteárselo habría que planteárselo

con este tema a decir que es que los demás claro no estamos en contra del fraude fiscal y por lo visto lo fomentamos y les décimos a los funcionarios que no hagan su trabajo pues no sé por qué no nos denuncia a todos empezando por los funcionarios

hasta que no ha llegado usted aquí a hablar del fraude fiscal aquí no se ha hecho nada

de donde viene de qué planeta viene si no conoce a nadie que se le haya inspeccionadoen los últimos

hasta cinco veces al mismo hasta cinco veces y algunos tres veces y otros dos veces y lo que también conozco es que hay algunos que no se les ha inspeccionado nunca pero fíjese si se ha hecho demagogia

foral de turno porque por supuesto eran los que más posibilidades tenían de cometer fraude como no tienen un sueldo público con las retenciones y los ingresos o sea alguien también como usted muy preocupado en la lucha contra el fraude fiscal

vamos a destinar inspectores fiscales a que investiguen a los diputados forales gran aportación en la lucha contra el fraude fiscal

a ver cuánto fraude fiscal cometen los funcionarios si algunos de ustedes dejan de hacer demagogia y de verdad les interesa la lucha contra el fraude fiscal si tienen algo que proponer de verdad útil ya saben dónde tienen que ir

no hace falta que vengan aquí vayan a inspección eskerrik asko damborenea jauna

me temo que la representante del partido nacionalista vasco dirá en el turno de réplica que el fraude fiscal no es un problema

en absoluto le digo que el fraude fiscal es un problema antes le he leído

el programa electoral con el que nuestro partido se presentó a las elecciones y gracias cual recibimos el voto de la ciudadanía y estamos aquí

esto está bien claro y no es una cuestión no es un cambio de opinión o de posicionamiento político debido a la necesidad en absoluto es previo y con este principio concurrimos a las elecciones naturales

los principios de convivencia fundamentales de la ciudadanía

cuando su problema es solo usted usted asume una iniciativa que no la consulta con nadie obviamente

y plantea a esta cámara que se pronuncia sobre que en los cuatro primeros meses de este año

comparezca el consejero y los diputados de hacienda de las diputaciones forales nosotros vemos eso

y no tenemos ningún problema con lo que usted plantea fíjese si no tenemos ningún problema que nosotros no vinimos aquí a ver si nos daban permiso

forales de hacienda sino que directamente solicitamos

su comparecencia y efectivamente como se ha señalado vino la diputada de hacienda de gipuzkoa

todavía no tiene como tal vida propia sino que son los grupos parlamentarios y fue el grupo socialista quien lo pidió vino

fue sincera en lo que a mí más me preocupaba y lo que menos me pudo explicar que es

un tiempo en el que las tres diputaciones forales hicieron una carrera rápida

más recursos y se confundían a nivel informativa lo que eran expedientes con resultados

que pasáramos de la publicidad a la realidad y que por lo tanto supiéramos exactamente qué es lo que se estaba obteniendo en esa lucha contra el fraude fiscal y la explicación fue

unos aquí otros allá y por lo tanto no puedo concretarlo la diputación de álava dijo que

en las juntas generales que se pidiera allí la información

la diputación foral de bizkaia hizo un numerito diciendo que

en las competencias en fin eran momentos previos a que se hubiese llegado en aquel pleno de fiscalidad que forzamos nosotros a que se realizara y a que tuviera consecuencias cuando

planteaba que era imposible esto de la lucha conjunta de la interconexión

nosotros tenemos un camino recorrido un camino práctico con un resultado que es el que acabo de señalar pero un camino no sé venir aquí a pedir permiso para eso si usted cree que lo tiene que hacer viene y lo plantea

por qué vamos a presentar una enmienda si no tenemos ningún problema con su propuesta es más el partido nacionalista vasco cuando confecciona su enmienda

alternativa nos la ofrece para que la suscribamos y no la hemos suscrito

lo que plantea como enmienda el partido nacionalista vasco también es posible de acordar cualquiera de las dos

yo les he dicho a usted y a usted que se pusieran de acuerdo y que en lo que se pusieran de acuerdo

fíjese que es lo que estamos haciendo y sale aquí como un puma y dice no sé cuántas cosas y la culpa de todo la tengo yo oiga señor maneiro en fin

claro es que en fin nosotros teníamos

y de ver cosas usted al final ha llegado a una

ratificamos lo que acordamos instamos a que se trabaje y pedimos que se informe cuando toque en fin perogrullo

bien señor maneiro usted en la réplica ha hablado

pero a la vez indica que el partido nacionalista vasco no cree que el fraude fiscal sea un problema la señora gorospe le ha contestado lo que su grupo considera el señor damborenea insiste en que esto ya pasa que no cree en un plan conjunto señor maneiro con quién ha firmado usted esta enmienda transaccional

que ya se está haciendo y por lo tanto con lo que tenemos nos es suficiente señor maneiro usted ha traído esta iniciativa aquí en otras ocasiones como usted sabe mucho mejor que yo porque usted estaba aquí

en febrero del dos mil doce el veintitrés de febrero si no me equivoco trajo usted a este

una moción en la misma línea y esos dos partidos le dijeron que nasti de plasti

y va usted y firma con ellos no le tengo que recordar con quién acordó usted

dónde estaba cada uno dónde está y dónde estará pero oye

pues alegría pero sinceramente señor maneiro creo que esa no es la vía se trata de otras cosas

plantéeselo señor maneiro sinceramente eta

desde que aparece la terminología de sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía date por perjudicado o

egunero erabakitzen jarraitu nahi dugu hori da gure desira el grupo nacionalista ha presentado según sus propias palabras una proposición no de ley sobre la actualización del autogobierno como expresión de la voluntad política del pueblo vasco eso que en otras partes llaman nuevo estatus político aunque sigamos sin saber qué hay detrás de esa afirmación que no han querido concretar en ningún momento

desde el principio para dejarlo bien claro qué es lo que pretendemos con la puesta en marcha de esta ponencia parlamentaria

muy sencilla en la que creo que todos debiéramos estar de acuerdo que pongamos en valor lo mucho que hemos construido todos juntos

en nuestras manos una enorme capacidad de autogobierno una de las mayores del mundo cuántos países hoy están mirando a euskadi con envidia tenemos un enorme derecho a decidir con el que

la convivencia y el desarrollo de la ciudadanía vasca y creo que todos podemos sentirnos razonablemente satisfechos de lo que hemos conseguido en este tiempo este primer ejercicio de reconocimiento es fundamental

agradecidos sino porque no se puede llegar a ninguna parte si no se tiene en cuenta el punto de partida el punto de partida señor egibar no es esta proposición no de ley

el punto de partida nuestro punto de partida es un magnífico estatuto

y ya sé que en estos años de funcionamiento hemos podido ver cosas que no funcionan como debieran desajustes que hay que arreglar cuestiones que pueden ser manifiestamente mejorables pero hacia afuera y también hacia adentro

una ley de aportaciones absolutamente disfuncional mecanismos poco claros de coordinación entre instituciones esto también tiene que ser corregido porque se trata de eso se trata de corregir se trata de mejorar de avanzar en lo que tenemos para conseguir construyendo

un país mejor entre todos no unos contra otros por lo tanto buscando siempre el acuerdo

es muy importante saber qué es lo que queremos lograr cuando pretendemos revisar lo que tenemos

los socialistas queremos que en el centro de todo estén los ciudadanos y las ciudadanas no otras entelequias

los ciudadanos y las ciudadanas ya sé que a usted no le gusta mucho este término

extranjero francés no sé si es que a usted le gustaría más que volviéramos al siglo diecisiete donde las personas

pero a nosotros nos gusta el concepto de ciudadanía porque el ciudadano o la ciudadana

la poseedora de los derechos sociales y políticos y nos gusta hablar de sociedad vasca

todas las personas que habitamos este país y a nadie se le pregunta su ideología su religión o su identidad

somos y juntos construimos la comunidad política que llamamos euskadi por eso no queremos proyectos en los que no quepamos todos no queremos participar de una construcción nacional que pretenda uniformarnos con una sola identidad y el que no la acepte excluido porque somos irreduciblemente sociales somos

nos diga cómo tenemos que ser ni si somos buenos vascos o malos vascos si no comulgamos con algunas ruedas de molino

somos vascos o vascas cada uno a nuestra manera y lo que exigimos es el respeto a esa diversidad porque es una de nuestras señas constituyentes

y no como la forma de imponer una sola una determinada concepción de lo vasco

para personas diferentes y quien pretenda lo contrario quien pretenda devolvernos al siglo diecisiete nos tendrá

y hablaremos de soberanía pero la soberanía ya no es lo que era

ya no está en un solo sitio la nueva forma de soberanía esta aquí entre nosotros en el parlamento vasco pero también está en el congreso de los diputados

como los son los diferentes ámbitos políticos sociales en los que nos desenvolvemos la soberanía tiene que estar también y debe de ser también compartida y buscar soberanías exclusivas

es simplemente ir en contra de la realidad en contra de la historia y en contra del futuro por eso quien pretenda levantar esas fronteras por muy soberanas que sean

todo eso se está transformando a nuestro alrededor la economía está globalizada la información

pero también en diferentes lugares del mundo y a nosotros nos toca crear

para esa nueva realidad para este nuevo siglo un entramado que forma un estado más amplio multinivel

también es estado todos somos parte de una nueva realidad institucional

y les pido que se sumen a esta tarea proponer nuevos estados independientes no solo fractura a la sociedad y enfrenta a unos ciudadanos con otros

que tenemos que gobernar y por eso la independencia nos tendrá también en frente su propuesta habla de actualizar el autogobierno y estoy de acuerdo pero no solo eso queremos modernizar el autogobierno

circunstancias pero también queremos modificar la constitución para integrar los nuevos autogobiernos en la gobernanza común

para hacerlas más democráticas y para poder ser partícipes de verdad de las decisiones que nos afectan podemos ignorar los cambios

imponiendo y es mejor que seamos nosotros los que actualicemos nuestro autogobierno nuestro modelo político nuestro modelo territorial y lo adaptemos a la nueva situación que ser espectadores de unos cambios que nos imponen otros

de cómo modernizar nuestro marco político para hacerlo más permeable y abierto no más cerrado y opaco de cómo garantizar nuestra presencia en los diferentes foros en los que se adoptan decisiones que nos afectan no sobre cómo nos encerramos en nosotros mismos

o rechazando nuestra pertenencia a otros ámbitos más amplios de cómo garantizamos las libertades de todo esto queremos hablar y lo queremos hacer en público porque es un debate en el que nos jugamos el modelo institucional

y queremos hacerlo claro que sí siguiendo las reglas del juego cumpliendo los requisitos legales que marcan el recorrido para hacer los cambios que pretendemos

la democracia no es solo un juego de mayorías y minorías es también y alguno diría sobre todo el respeto a las reglas el respeto a las normas y a las leyes que son las que garantizan mi libertad

porque son el control del poder lo ejerza quien lo ejerza por eso sobre estas bases

un esfuerzo para construir juntos las nuevas instituciones que den al acomodo necesario a la siguiente generación es hora

y decidan sumar esfuerzos para construir un nuevo marco institucional

más acorde con lo que está por venir que anclado en no sé qué esencia milenarias

su intervención ha sido casi exclusivamente hablando del pasado la mía del presente y de lo que tenemos que hacer para adaptarnos a la nueva realidad

pero los socialistas vascos también queremos decidir pero no solo una vez y para siempre

en euskadi en españa y en europa porque eso es lo que va a ampliar nuestra capacidad de influencia y de su mano

cualquier actualización tiene que servir para mejorar lo que tenemos no para retroceder por muy a gusto que se sienta algunos y el estatuto de gernika pone en nuestras manos

define el marco en el que podemos convivir todos pensemos lo que pensemos o nos sintamos como nos sintamos y representa el pacto entre diferentes que ha sido capaz de construir este país por lo tanto mejorar es garantizar el autogobierno consolidar y reforzar

y recuperar los pactos entre los diferentes es decir hablemos debatamos y sobre todo acordemos para que lo que decidamos tenga como mínimo el mismo respaldo el mismo consenso que suscitó nuestro estatuto porque de lo contrario sería retroceder
eskerrik asko lópez jauna y eso también nos tendrá en frente porque lo repito este país tenemos que hacerlo entre todos

a todos tengo que comenzar confesándoles que asistimos a este debate con cierta expectación no al que se produce hoy que también en cierta medida sino el que abre a partir de hoy

se va a constituir y con la declarada voluntad de aportar de aportar no solo nuestra opinión hoy y en la ponencia sino de aportar también algo de claridad en lo que entendemos que está necesitado

de mucha claridad en los posicionamientos comenzaré con dos cuestiones previas

en el texto origen de este debate y tampoco en la transacción no se ponga en valor expresamente por parte de quien ha gobernado siempre en la euskadi constitucional salvo cuatro años

el estatuto de autonomía lo que ha supuesto y lo que supone para los ciudadanos vascos lo que ha supuesto para nuestro progreso para la modernización objetiva de euskadi en estos casi cuarenta años lo que ha supuesto el estatuto de autonomía que nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de autogobierno

que euskadi y se obvia intencionadamente

como sujeto político solamente ha existido

una españa democrática y constitucionalmente legitimada y segundo un acuerdo entre vascos solo cuando se han dado esas dos condiciones euskadi como sujeto político tal y como lo conocemos hoy ha existido mil novecientos treinta y seis unas circunstancias dramáticas

por eso llama la atención nos llama profundamente la atención

estas dos cosas que se obvian se obvian por desprecio a algo que debería ser puesto en valor y lamento señor

no aparezca sino que hoy quien ha disfrutado objetivamente de esas cotas de autogobierno porque además ha gobernado esta tierra gracias al autogobierno del estatuto de autonomía no lo reconozca

los males que aquejan o algunos de los males que aquejan el ejercicio de la política moderna es la utilización desmesurada

que empañan la necesaria claridad del debate y por lo tanto también obvian y apartan el rigor necesario de los debates el planteamiento de este debate hoy está plagado de eufemismos por parte del grupo proponente por parte de sus dirigentes políticos y por parte en las semanas precedentes

ustedes eluden interesadamente avanzar una propuesta concreta para según sus palabras las palabras del señor lehendakari evitar división y enfrentamiento lo que avanza también que las buenas palabras por mucho que intenten disfrazarse esconden la visión

de este camino que hoy emprendemos poco propicio por lo visto al consenso según sus previsiones y llama la atención y justifica también la necesidad de superar desde hoy mismo la utilización de eufemismo

retóricas y literarias que tienen para orillar algo que en un estado democrático y de derecho debería de ser ineludible y de sencilla formulación la adecuación a la ley de cualquier procedimiento de reforma de la propia ley usted

pero no lo dicen ni una cosa ni otra con claridad ahora hablaremos

y el lehendakari nos invitan a los partidos representados en esta cámara a consensuar eso que al mismo tiempo han llamado actualización reforma nuevo estatus al mismo tiempo lo llaman de diversas maneras

y dependiendo de quién lo manifieste eludiendo arriesgar un proyecto propio eludiendo ser explícito eludiendo ser claros

y se traslada la concreción su concreción

a este parlamento se abre un camino ustedes abren un camino a la espera de acontecimientos extraños y a que los vientos sean favorables y no nos confiesan lo que ustedes realmente quieren no nos lo cuentan es decir parece que no hay un proyecto propio o sí lo hay hablemos claro y sin eufemismos y espero que se interpreten estas palabras como lo que son

hablemos claro para entendernos desde ya en lo básico porque eso va a ayudar y nos va a ahorrar

ustedes señor egibar son independentistas ustedes y estos señores también hay un matiz una diferencia y es que ellos quieren la implantación además

pero ustedes son independentistas tienen fiada su misión en política a la consecución de la independencia de euskal herria

todos los pasos que den todas las propuestas que hagan en justa coherencia estarán encaminadas al logro de ese objetivo

tan solo descriptivo para alcanzar ese objetivo a veces pisarán el acelerador otras veces contemporizarán

y en otras no tendrán problema en denunciarla o en rechazarla a veces serán claros

pero todo siempre todo siempre estará

a lo de siempre pase lo que pase sean las circunstancias que sean su objetivo es la independencia de euskal herria

para justificar la presentación de esta proposición no de ley para justificar la constitución de la ponencia

lo fue también antes y así lo afirmó el señor ibarretxe

y antes fueron otros momentos para ustedes siempre es el momento

siempre es el momento para dar pasos hacia la independencia hablemos claro lograr esa independencia su pretensión

está por encima incluso de su vocación de servicio público que no se la niego obviamente pero es una pretensión que está por encima de cualquier otras razones de cualquier otra motivación

les dará igual nuestra historia de convivencia y progreso y de vascos con el resto de españoles les dará igual que la euskadi de hoy de su progreso lo que de modernidad y pujanza tiene se deba también

y trajeron una euskadi con ellos mejor pero más allá de la historia que para alguno será determinante según como la interprete según cómo la cuente y cómo decida vivirla para otros no lo será tanto lo peor

es que les da igual también el futuro el rumbo del mundo les dará igual defender seguir defendiendo machaconamente una idea del siglo diecinueve en un mundo que experimenta tal evolución y cambio que ya no permite vivir de sueños del pasado que ya no tiene respuestas fáciles

es un mundo mucho más complejo que no se puede explicar y que no admite respuestas del siglo diecinueve señor egibar les dará igual la constante evolución de los estados nación les dará igual que europa busque derribar muros entre ciudadanos

personal por encima de la colectiva en un mundo cada vez más abierto e interrelacionado todo esto les va a dar igual y otras muchas más cosas la incertidumbre que se genera la preocupación la tensión política la tensión ciudadana

porque su objetivo es la independencia de euskal herria y todo

si coadyuva a la obtención de ese objetivo y por eso es tan importante la ponencia que se va a constituir

porque vamos a tener la oportunidad en el seno de esa ponencia de confrontar dos modelos dos formas de entender euskadi no tanto del pasado sino cómo queremos proyectar euskadi hacia el futuro y yo le adelanto cuál es la nuestra señor egibar para que porque claro también nos echa en cara que vamos a defender cada uno nuestra posición faltaría más que defendiéramos la posición del pnv

creemos que euskadi tiene un futuro apasionante esperanzador

es cierto que ese futuro está plagado de retos y de dificultades porque el mundo como les decía antes es cada vez más complejo más competitivo y a la vez también

si sabemos situarnos correctamente si sabemos aprovechar el inmenso potencial que tenemos

que ese futuro de euskadi pasa por la interdependencia por la colaboración pasa por el entendimiento por fortalecer los evidentes lazos culturales históricos económicos etcétera etcétera que nos unen con el resto de españa

porque aquí el tamaño sí que importa señor egibar en esta ocasión sí que importa

pero importa mucho más la certidumbre importa mucho más la seguridad jurídica la observancia de los marcos de convivencia

de representar a todos los ciudadanos seamos precisamente conscientes cada día de eso de que representamos a todos los ciudadanos no a una parte

no a unas identidades excluyentes ni separadas representamos a todos los ciudadanos y por eso termino ya

al partido nacionalista vasco en especial a todos el general pero a ustedes en especial

aprendamos de esos errores que nos llevaron a momentos de tensión política y social irrespirable

tenemos un ferrari que es el autonomismo que es es la autonomía que es euskadi y lo están conduciendo como un seiscientos aprovechemos

de nuestro estatuto de autonomía mejoremos lo que haya que mejorar reformemos lo que haya que reformar pero aprendamos del pasado señor lehendakari no volvamos a incurrir en los errores de división y de tensión eskerrik asko sémper jauna dentro de la ley todo es posible fuera solo hay un abismo

nos lleva a un callejón sin salida muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

solo hay nuevo estatus para la comunidad autónoma vasca o para nafarroa garaia o para ipar euskal herria si este contiene

el derecho a decidir porque si no lo contiene si no lo contempla no es nuevo estatus es el viejo remozado es el viejo parcheado

muchas gracias presidenta buenos días de nuevo en la justificación de su iniciativa el partido nacionalista vasco dice algo que es cierto y que nosotros consideramos que es muy interesante dice expresamente lo siguiente

a las virtudes y deficiencias del modelo autonómico vigente y sobre los cambios estructurales que deben introducirse en el mismo con objeto de asegurar su viabilidad general

así es a día de hoy el estado autonómico está puesto en cuestión y algo tiene que ver por cierto las iniciativas planteadas y el argumentario expuesto por upyd la cuestión

autonómico qué es lo que deberíamos hacer para garantizar un estado autonómico que sea viable que sea eficiente y que sea eficaz esto es lo que escribe el partido nacionalista vasco en su justificación y nosotros para dar respuesta a esto que

lo que hacemos es plantear la enmienda que hemos planteado que es en nuestra opinión lo que debería hacerse en el conjunto del país para modernizarnos

a diferencia de otros portavoces incluso algunos de los que proponen que se ponga en marcha a diferencia de esos portavoces nosotros sí tenemos claro hacia dónde tenemos que ir y qué modelo defendemos qué es lo que nosotros proponemos con esta enmienda reformar el modelo autonómico efectivamente no para contentar a los nacionalistas esto es muy importante y esto va especialmente dirigido al grupo socialista no para contentar a los nacionalistas

no se pueden acomodar porque los nacionalistas nunca van a estar cómodos porque los nacionalistas nunca van a conformarse con lo que tienen porque los nacionalistas son

pero nosotros no vamos a proponer nada con el objetivo de acomodar a los nacionalistas lo que vamos a hacer y es lo que proponemos es reforma para defender el interés general el bien común lo que a todos nos une esto es lo que nosotros

reformar el modelo autonómico para corregir las deficiencias y las duplicidades existentes para defender el interés general y para defender la igualdad para defender también dentro del país donde vivimos la igualdad

la igualdad fiscal también supongo que aquí los progresistas o los que se consideran de izquierdas estarán de acuerdo igualdad ciudadana igualdad fiscal dentro del estado del que somos ciudadanos es muy importante señalar que a los nacionalistas les interesa caracterizado por la corrupción las chapuzas y los enfrentamientos territoriales también por esto hay que corregir el estado en el que vivimos ya digo no para contentar a los nacionalistas esto es algo imposible sino para defender el bien común el interés general nuestra propuesta es un estado federal simétrico y

un estado federal simétrico y cooperativo conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias donde el estado pueda tener una serie de competencias indelegables para garantizar el interés general y la máxima igualdad

reformar la arquitectura institucional de euskadi algo que sigue sin hacerse y que no se ha planteado nunca en los últimos años

de la ley de territorios históricos y aprobación cuanto antes de una ley municipal para modernizarnos para garantizar también en euskadi la mayor

conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias supresión de las diputaciones provinciales y supresión de las diputaciones forales fusión de municipios nueva distribución de competencias entre europa el gobierno de españa

comunidades autónomas y municipios los recursos públicos debemos dedicarlos

no a mantener instituciones inútiles sino a dedicarlos a defender los intereses de los ciudadanos esta es por lo tanto nuestra enmienda también está en nuestro programa político que ustedes pueden leer esto es lo que hemos venido defendiendo en los últimos tiempos hace unos

leía un titular de un medio de comunicación que decía lo siguiente el partido socialista obrero español rechaza un debate territorial troceado para cataluña y euskadi y la señora elena valenciano decía que

no es una prioridad ni de la política ni de la sociedad vasca en fin observamos que el partido socialista de euskadi su propia vía para profundizar en el estado confederal y en las desigualdades territoriales cosa que en última instancia aprovechará el partido nacionalista vasco en su beneficio en todo caso sí que sería interesante saber qué es lo que propone exactamente el partido socialista de euskadi como aquí se ha dicho sabemos lo que proponen

habría que saber qué es exactamente o al menos aproximadamente lo que plantea el partido socialista si

si lo que propone para madrid o qué es exactamente lo que propone lo digo porque ustedes son los que han propuesto que se configure una ponencia por lo tanto ustedes deberán explicar qué es lo que cada uno de ustedes quiere sabemos ya digo qué es lo que proponen los nacionalistas dar pasos hacia la independencia y separarnos

lo que traerá como consecuencia o traería como consecuencia porque no se va a dar en ningún caso la ruptura de la convivencia y el enfrentamiento entre los ciudadanos evidentemente nosotros sí que vamos a estar en esa ponencia no solo para rebatir las propuestas del partido nacionalista vasco sino para defender las nuestras las que hemos defendido todos estos años

sabemos cuáles son las intenciones del nacionalismo vasco al proponer esta ponencia las conocemos perfectamente no es mejorar la vida de la gente las intenciones del nacionalismo

es avanzar hacia la independencia en fin

más competencias no podemos tener el siguiente paso ya sería la independencia eso también

proponen sabemos en todo caso qué es lo que propone el nacionalismo vasco avanzar hacia la independencia romper el país sacarnos de españa y de europa

quieran entrar en ese juego nosotros no vamos a hacerlo en ningún caso estaremos de quienes quieren romper la convivencia y de quienes quieran profundizar en la desigualdad

y estaría bien que ustedes los conozcan perfectamente la legalidad vigente y la propia democracia las leyes pueden cambiarse la constitución española puede cambiarse pero

establecidos y una cosa debe decírsele a los miembros del partido nacionalista vasco y eh bildu el derecho a decidir entendido como lo entienden los nacionalistas es decir el derecho a la autodeterminación

es una falacia y no se va a poder aplicar en ningún caso el modelo territorial del estado lo decidimos todos los españoles el cuerpo electoral no se puede fraccionar y el derecho a decidir corresponde al conjunto de los ciudadanos

abertzaletasunaren betiko gezurrak desmontatzeko esto es en nuestra opinión lo que debe hacerse estos son los cambios legales y estructurales que deben acometerse euskadi no necesita más nacionalismo necesita